y marca las pautas de trabajo a futuro eskerrik asko sémper jauna zurea da hitza

después de su primera intervención y habida cuenta de la actitud tradicional de la izquierda abertzale cuando se trata del partido nacionalista vasco que ustedes se arrugan

hay una expresión que es mucho lirín lirín y poco larán larán y entonces ustedes mucha indignación salen a esta tribuna diciendo cómo es posible que este gobierno mienta cómo es posible que utilice el dinero público en beneficio de parte

y no es la primera vez y no será la última y se arrugan porque es el pnv y porque son nacionalistas y a la hora de la verdad eso une mucho y ustedes

hoy podrían haber demostrado esa indignación con un hecho es votando a favor de la reprobación

en justa correspondencia con sus palabras y con su indignación de quien ha mentido en esta cámara y no lo han hecho oportunidad perdida txanda pasatu y señor

esto no se trata de compensar usted ha salido aquí es que le puede

es algo que le supera cuando sale a esta tribuna y mirando a los señores de bildu dicen y cuánto le dan en gipuzkoa noticias de gipuzkoa que no se trata de prebendas señor egibar que hay una ley que marca claramente

en base a qué criterios tiene que conceder subvenciones a unos y a otros

ni de bildu ni de nadie eso es algo que no terminan de entender las instituciones igual que el dinero público no son suyos y tienen que repartirlo con equilibrio y con equidad señor egibar a ver si en el año dos mil catorce ustedes terminan de entender eso

vienen los grupos de la oposición y se lo reclaman y se lo censuran y usted no ha sido humilde salvo que entendamos por humildad usted y yo cosas

porque su intervención aquí no ha sido la de alguien que acepta el error señor

una enmienda que lo que pide es cumplir la ley faltaría más o es que ustedes por ser el partido nacionalista vasco lo de la ley

pero cómo puede venir a esta tribuna y sustentar su intervención alegando oiga que ya vamos a cumplir la ley

este no faltaría más que tengamos que hacerles la ola y aplaudirles porque nos digan que van a cumplir la ley que este gobierno va a empezar a utilizar

a la hora de repartir el dinero público entre los medios de comunicación de verdad que esto es

podría haberse buscado usted algún defensor mejor señor erkoreka como tampoco es problema si el señor erkoreka es tonto o no que obviamente no lo es qué más nos da

que lo que el debate aquí es que nos ha engañado y que eso es censurable

de esa censura política más rotunda justificada absolutamente justificada porque estos señores y estos otros se arrugan porque es del partido nacionalista vasco y porque es el gobierno vasco que sino otro gallo cantaría porque si esto si mentir

alguien siendo del gobierno del partido socialista o del partido popular las intervenciones de estos señores y la suya misma hubieran sido completamente diferentes

el señor erkoreka nos ha engañado nos ha intentado engañar

y lo mínimo que ustedes deberían de haber hecho lo mínimo es responder con humildad pedir perdón a esta cámara que todavía no ha perdido nadie perdón a esta cámara y el gobierno también tenía que haber pedido perdón a esta cámara

aquí primero no se trataba solamente de reprochar que yo creo que ha quedado perfectamente claro al señor erkoreka una actitud que me parece absolutamente indecorosa

cuando llegamos a aquella diputación permanente convocada por la oposición y no a petición propia del lehendakari

entonces no nos cuente usted que no le dejamos ni expresarse al lehendakari y que hicimos no sé qué

lo que quisimos dejar claro toda la oposición fíjese usted que somos distintos y dispares es decirle a usted

ni siquiera de errores esto es una estrategia perfectamente establecida por este gobierno para dotar de más recursos a un grupo que tenía dificultades económicas con una

legal que no corresponde para nada ni a la ley de publicidad ni al comportamiento del código ético a ver si ahora resulta que todo esto viene trae causa de que

y de onda vasca casualmente se les olvidó indicar que estaban patrocinados por el gobierno vasco y que todos los departamentos del gobierno que colaboraron en la inyección de dinero casualmente se les olvidó también indicarles que tenía que figurar con ese supuesto patrocinio que ustedes dicen no es así

ustedes lo hicieron desde el gobierno con toda la intención de lo que hacían y después el problema es que les pillamos y entonces se encontraron con que a ver cómo salían del embrollo

pido disculpas y vamos a corregirlo pero la oposición

le pidió que recuperase el dinero entregado a ese grupo de forma irregular y eso es lo que le vamos a preguntar mañana desde el grupo socialista porque si no esto se quedaría

que pase más desapercibida pero no es eso de lo que se trata estamos hablando de comportamientos éticos

de este gobierno la transparencia llegue a ser verdad en algún momento y no solo mera propaganda y luego desde la buena voluntad señor erkoreka

del grupo parlamentario del pnv en el congreso donde se podía permitir determinadas licencias

que aquí usted no se las puede permitir porque usted aquí es el portavoz de un gobierno en minoría y su obligación no es fomentar incendios y echar gasolina al fuego sino todo lo contrario intentar cuajar consensos y sobre todo ser veraz cuando da informaciones

un pequeño repaso a la situación del comercio y vamos a intentar analizar desde nuestro punto de vista

el comercio vasco como todos sabemos y la verdad es que no hace falta hacer un estudio muy profundo porque la simple observación

bastante complicada es una realidad de persianas cerradas en nuestros municipios es una realidad de desmoralización entre el sector es una realidad muy complicada

más allá de la apreciación subjetiva que en este caso creo que es bastante evidente pero que puede fallar

los datos nos dicen los que tenemos de la comunidad autónoma vasca los últimos que tenemos de ikusmer

aumentaron un cero coma nueve por ciento en el segundo trimestre dos mil catorce

de prácticamente un uno por ciento pero recordamos que esta época coincide con una minúscula recuperación general y por tanto son unos datos que no nos pueden llevar a hablar de plena recuperación venimos de una situación muy mala de muchísimos trimestres encadenados de pérdidas de descenso del consumo y descenso de las ventas en el sector minorista

no nos lleva a poder ser optimistas y más cuando si analizamos otros datos posteriores

un fogonazo pasajero y que realmente el comercio afronta nuevamente tiempos difíciles no tenemos como decía datos de la comunidad autónoma vasca pero sí podemos ver informaciones múltiples de prensa y de múltiples portavoces de asociaciones comerciales del estado español

advierte una nueva desaceleración en el consumo y la posibilidad

leo rápidamente artículos de el país de septiembre diciendo

en los primeros meses del año la situación se ha dado la vuelta desde junio el índice del comercio minorista del ine en julio hablaba de una pérdida ya del cero coma cinco por ciento en tasas interanuales el responsable de la

de supermercados decía también en septiembre lo que nos están trasladando nuestros asociados es que el consumo se está frenando

hoy mismo estamos viendo en el periódico por ejemplo en el periódico el economista una noticia de hoy

piensan que se va a producir una ralentización y un deterioro de la situación económica por tanto como decía el director de otro lobby mención expresamente a asociaciones empresariales y lobbies

las propias asociaciones incluso las más entroncadas en lo que es es algo que se está reconociendo que el sector se estanca con una tendencia a la baja

pues bien ya tenemos los datos del último cis del último mes el cual ya se detecta que esa pérdida de confianza del consumidor existe ha descendido dos coma cinco puntos

que cómo dice el banco de españa en su informe sobre las previsiones a partir del tercer trimestre

es la previsión que se hace en el corto plazo por tanto tenemos un sector muy castigado y una situación muy deteriorada que a duras penas está frenando el desplome de ventas y amenazado por una enorme incertidumbre un sector del comercio

y porque está tan mal el sector del comercio es porque los horarios

pues vamos a ver también que dicen las personas que trabajan en este ámbito

los datos que están publicando y las previsiones que tenemos esto es de septiembre confirman nuestro planteamiento de que cualquier subida del iva iba a ser desastrosa para el consumo

que penaliza a los pobres y beneficia a los ricos que es la que está poniendo en marcha el gobierno central

en el sector del consumo y de la distribución la política fiscal y dice más para que la economía repunte tiene que haber incentivos al consumo privado y con los consumidores puedan recuperar el poder adquisitivo otro representante del sector

y con la caída de población que se está registrando el consumo ha vuelto a frenarse entonces nosotros nos planteamos a ver si el problema del comercio va a ser la crisis

y no es que las tiendas estén cerradas los domingos está el sector a favor de la liberalización de horarios el sector como decía antes de forma genérica está absolutamente en contra no voy a abrumar

de razones de declaraciones de afirmaciones públicas con datos en los cuales las como decía antes las asociaciones representativas

los horarios en el país vasco y como decía no voy a abrumar con las citas pero sí voy a resumir un poco en qué se basan para estar en contra de la ampliación de horarios porque perjudica la conciliación familiar porque perjudica al pequeño comercio porque perjudica a los pueblos frente a las capitales perjudica el empleo en cantidad y calidad

y una precarización del empleo en las grandes superficies y porque provoca una pérdida fiscal al favorecer empresas

funciona la liberalización para crear empleo no funciona el año pasado el año dos mil trece madrid que tiene liberalizada por completo los horarios comerciales perdió

con respecto al año anterior por encima de la media de pérdidas del estado español los consumidores tampoco lo quieren un estudio de ikusmer hablaba que el noventa y uno por ciento de los encuestados

las zonas turísticas no son la solución el abrir más tiempo las tiendas no va a solucionar el problema que tiene el comercio los

lo que sí se puede dar porque el comercio pequeño no iba a abrir aunque tuviera la posibilidad porque de hecho ya tiene en determinados momentos la oportunidad y no abre porque no es rentable lo que sí puede haber es una suerte de horario en las cuales las grandes superficies pueden abrir

en festivos para nueve al pequeño comercio

el pequeño comercio eso podría ser letal antes de la crisis compraban en rebajas un veinticinco por ciento de las personas ahora el cuarenta por ciento de las compras

para hacer las compras también podrá esperar del sábado al lunes para hacer las compras sin que sea necesario que este abierto los festivos la cuestión de las zonas de gran afluencia turística como decía

y un nuevo golpe al sector del pequeño comercio y por eso ya finalizo voy a repetir unas palabras del ces del consejo económico social vasco que decía el ces vasco quiere poner de manifiesto

e inoportuna una mayor liberalización de horarios y días de apertura de los establecimientos comerciales porque es discutible su impacto positivo en el consumo y la creación de empleo

no considera adecuada la tramitación de este anteproyecto de ley de cuarta modificación de ley de actividad comercial

en información pública el anteproyecto de ley de cuarta modificación de la ley de actividad comercial el expediente

de impacto en la empresa y un informe de la comisión consultiva de consumo de euskadi y este anteproyecto

las denominadas zonas de gran afluencia turística y habilitaban la segunda disposición adicional al gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias en materias de horarios comerciales en concreto la habilitación para establecer

los límites máximos del horario global así como para la determinación de los establecimientos comerciales a los que les afecten y aquellos otros que puedan estar en situaciones especiales se dice en ese informe jurídico del anteproyecto que su contenido versa sobre materias sobre las cuales la comunidad autónoma del país vasco ostenta competencia exclusiva respetando el contenido básico de las disposiciones estatales

fuimos informados antes del verano por organizaciones del sector comercial vasco de las alegaciones que en el trámite de información pública de ese anteproyecto habían emitido y que de forma resumida podemos concentrarla en cinco por un lado

veinte barra dos mil doce de trece de julio ya que invade las competencias del comercio de euskadi

en esta modificación legislativa no existe un informe de evaluación de impacto en función del género tratándose como se trata de una modificación legislativa para un sector que ocupa preferentemente a mujeres tercera alegación no consta en la realización de informes preceptivos y trámites de información

del consejo económico y social de la oficina de control económico normativo de la comisión asesora jurídica de la autoridad vasca de la competencia de landaberri

cuarta alegación la memoria económica elaborada para la tramitación de esta modificación de ley tiene como base el documento denominado impacto para la declaración de zonas de gran afluencia turística en la distribución comercial minorista de la comunidad autónoma de euskadi

parcial y que desconoce datos objetivos sobre el flujo económico comercial por otro lado el pasado veinticinco de junio la comisión ejecutiva de eudel enviaba al director de comercio del departamento de desarrollo económico y competitividad un certificado

de cuarta modificación de la ley de actividad comercial y esas alegaciones que formulaba y certificaba eudel se pueden concretar en tres

turística aquella o aquellas que limitan o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas o constituyan una ciudad fronteriza otra de las alegaciones

en relación a las solicitudes para la declaración de zonas de gran afluencia turística de la audiencia de la comisión consultiva del comercio ni del consejo consultivo de comercio que no se consulte que no haya audiencia y por último que se modifique la previsión legislativa al objeto de otorgar al silencio administrativo carácter positivo por último y ya lo ha comentado también el portavoz de eh bildu

anteproyecto presentado por el departamento de desarrollo económico y competitividad y solicitaba la retirada del texto legal propuesto bien pues con estos antecedentes

estamos a favor de la presentación deun recurso de inconstitucionalidad contra esa liberalización de los horarios comerciales que promueve el real decreto ley veinte barra dos mil doce

que este real decreto vulnera las competencias que tiene en este caso el país vasco en materia de comercio y que además no responde al interés general el comercio vasco es un comercio sostenible cercano equilibrado

y el empleo en euskadi y creemos que las disposiciones normativas

lo ponen en riesgo más que ayudarlo además debo decir que tenemos serias dudas en cuanto al impacto positivo que tanto en el consumo como en la creación de empleo

todo este compendio de disposiciones normativas estatales y sí creemos en cambio que genera desasosiego e incertidumbre en el sector comercial

por lo que conocíamos de él de forma oficial nos ofrecía serias dudas de que fuera a paliar los problemas que han planteado diversas entidades y asociaciones del sector comercial vasco y de ahí que nuestra enmienda propusiera su retirada hemos mantenido reuniones con el gobierno vasco y se nos ha dicho por parte del propio gobierno y le creemos que el proyecto de ley se ha debatido en el foro consultivo de comercio foro en el que está el sector comercial representado también los sindicatos eudel y las diputaciones forales

todas las alegaciones que se han formulado e incluso aquellas que se han considerado razonables se van a incluir en el proyecto de ley se nos ha dicho también por parte del gobierno vasco que

de zona de influencia turística y también va a ser necesario

en el municipio del sector comercial en el municipio y los socialistas vascos consideramos que estas dos condiciones que no estaban en ese anteproyecto de ley no solo son importantes son claves son fundamentales

legal que a nuestro modo de ver tienen que contemplarse los socialistas sí entendemos necesaria la existencia de una regulación propia autonómica en el país vasco que establezca con claridad cuáles deben de ser las reglas de juego para todos los municipios

las mismas para todos por lo tanto es necesaria esa regulación legal que quede claro y consideramos también que el gobierno vasco

sociales y sectoriales debe trasponer en esa regulación autonómica las conclusiones que más acuerdos y que más consensos hayan generado

solo en ese caso podremos evitar en euskadi tener una regulación autonómica que sea peor como remedio que la enfermedad que es lo que está ocurriendo a nivel

que es necesario conciliar los intereses de los ayuntamientos en lo que concierne al desarrollo de su potencial económico conciliar digo esos intereses

que como decía antes es un comercio cercano un comercio de calidad un comercio que es sostenible y que además es un comercio equilibrado y yo creo que se debe entender esa regulación autonómica

de desarrollo del propio sector comercial y también del sector turístico por qué no siempre y cuando esa regulación venga precedida del diálogo del contraste de la información veraz y que se produzca por los cauces democráticos y sin imposiciones las leyes se aprueban aquí en este parlamento vasco las leyes autonómicas

de aportaciones discusiones y propuestas que suman voluntades y que suman mayorías y por eso es aquí en el parlamento donde podrían encauzarse mejor que en ningún otro sitio los desajustes que pueda presentar el proyecto de ley

en la negociación con el grupo nacionalistas vascos debe contar

con el informe favorable de eudel como una entidad que está por encima de consideraciones partidistas

de todos los ayuntamientos de euskadi y más en este caso cuando se trata de una materia y de un ámbito como el comercio que es importante en todos
y cada uno de los municipios vascos nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

el turismo con conocidas excepciones como la de donosti por ejemplo es una industria relativamente joven en euskadi especialmente

es joven pero pujante y con una tendencia al alza

y en su conjunto aunque son la mayoría microempresas

es la consecuencia del desarrollo de las comunicaciones de todo tipo de la sociedad del ocio como saben según la organización mundial de turismo

lo que representa una clara oportunidad para aumentar la

de ser más competitivos y profesionales como saben también euskadi ha recibido

entradas aproximadamente de turistas en el conjunto de alojamientos turísticos entre junio y agosto de este año

gracias a un crecimiento del ocho coma ocho con respecto a los datos de hace cuatro años además el cuarenta y cuatro por ciento de esos turistas han sido extranjeros el turismo no solo tiene unos efectos positivos como por ejemplo en la marca país

gracias a la tensión competitiva que generan las mayores exigencias tanto generales como segmentadas de nuestros visitantes

de negocio en los establecimientos estrictamente hosteleros y culturales tiene un efecto y también en sentido positivo

es por eso que todos los planes de impulso del turismo de todas las administraciones

a otros sectores que se ven influenciados positivamente por el turismo tomemos por ejemplo el plan estratégico del turismo vasco dos mil veinte cuya visión señala que como industria el objetivo de los actores públicos y privados es generar empleo y contribuir a impulsar la actividad económica de otros sectores en euskadi y es que resulta evidente

una relación directa entre el número de visitantes y el grado de pernoctaciones el nivel de gasto de los mismos y el comercio urbano es decir entre el turismo y el comercio

sino en nosotros mismos y en lo que hacemos cuando viajamos a otras ciudades países o continentes eso nos puede dar una pauta relativamente significativa de lo que estoy intentando exponer

debería analizar cuidadosamente si el turismo y su creciente evolución al alza puede ser una fuente de negocio y de creación de riqueza para el sector y más si cabe en esta coyuntura económica efectivamente difícil que vivimos desde hace ya demasiados años y

y al comercio también como ha señalado el señor casanova eso sí y lo quiero decir muy claramente nosotros

con una liberalización total de horarios y calendarios para el sector comercial con motivo de la actividad turística pero vemos interesante para los dos sectores regular esta posible conexión entre el turismo y el comercio

esta regulación la debemos de hacer desde aquí desde el parlamento vasco teniendo en cuenta las características propias que tienen estos dos sectores en euskadi y tercero

que podamos aprobar en este parlamento debe contar desde nuestro punto de vista y en todo caso con la aprobación de los ayuntamientos

aprovechar esta posibilidad se trata en definitiva y termino ya de avanzar pero avanzar todos juntos

en beneficio de la sociedad y del propio sector comercial creemos que este el que acabo de exponer es un equilibrio adecuado que redunda y puede redundar

upyd parece

votaré a favor de ese acuerdo gracias eskerrik asko maneiro jauna

también para anunciar que votaremos a favor de esa enmienda de transacción pero es verdad que sin querer extenderme en el debate porque tendremos ocasión de discutir

la posición de cada uno y cada grupo en relación con la libertad

yo le tengo que decir señor casanova que la matraca que nos ha traído usted aquí pensando que todos los males le vienen a usted de madrid oiga este es un discurso que ya

tiene un discurso usted en relación con el comercio como de los ochenta y las cosas han cambiado mucho han evolucionado mucho mire yo he tenido un pequeño comercio en mi familia ha estado ligada al pequeño comercio

nos llevaría a la ruina nos llevaría a todos a la ruina mire esta mañana nos ha dado tiempo a hablar de algunas cosas en relación con

los dineros que utiliza este gobierno en subvencionar a unos a los amigos etcétera

en vez de estar pensando que todos los males nos vienen de madrid y que si la apertura de los horarios y la libertad esa es mala siempre para usted la libertad siempre es mala este gobierno dedica más dinero

que todo lo que dedica en apoyar a los pequeños comercios que lo están pasando mal mire si tiene usted la posibilidad de presentar aquí una iniciativa porque dedicamos más dinero

que en apoyar a todos los pequeños comerciantes de esta comunidad ya está bien

y a utilizar la demagogia para atacar sin argumentos a un gobierno el de españa que lo único que ha tratado es de adecuar una directiva europea señores

a usted no les vienen de madrid que no le viene los problemas de madrid lo que pasa es que ustedes nos quieren sacar de europa es que es una directiva europea la que habla de libertad

en materia de comercio es europea y mire el gobierno de españa

en el que solo se ven afectadas los municipios de más de cien mil habitantes

pernoctaciones en el año inmediatamente anterior

o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más

pasajeros es decir en el país vasco solo dos ciudades señor casanova san sebastián y bilbao

el que tiene que hacer un planteamiento en relación con eso el ayuntamiento de bilbao en relación con esa cuestión ya se ha posicionado y todos los grupos la inmensa mayoría de los representantes de la ciudadanía bilbaína ya se han posicionado a favor de regular esto

de especial influencia turística y además han delimitado y han limitado a unas fechas concretas esa posibilidad

partido nacionalista vasco partido socialista y partido popular el único que se opuso es bildu

la propuesta inicial del pnv no se circunscribe a bilbao y san sebastián es que el proyecto del pnv el anteproyecto de esa reforma de esa propuesta de ley

que venga la ley y nos retratamos nos retratamos para saber

y al mismo tiempo proteger al pequeño comercio y sobre todo el debate de hoy no de los ochenta cómo

euskadi no recibía los turistas que recibe hoy señor casanova y claro si después señores del grupo socialista y también señores del partido nacionalista vasco porque han tenido competencia en materias de comercio en los últimos

el gobierno vasco y después de haber castigado a los pequeños comerciantes en los cascos de las ciudades que se han visto muchas veces desertizados

por la llegada de las grandes superficies ahora a esos pequeños comerciantes que las han pasado canutas

a esos que han visto como parte de su clientela se iba a comprar

de en determinadas fechas abrir porque les están pasando los turistas que vienen de fuera

delimitar si pueden ser los pequeños los medianos y los grandes no

en el año y en qué zonas concretas pero tener oportunidad de negocio y a esos comerciantes que lo están pasando mal no permitirles darles una oportunidad

me parece que eso es limitar limitar oportunidades la oportunidad de que esos comercios salgan adelante porque esos comercios tienen la oportunidad

que en su actividad comercial la de los supermercados no hay negocio un domingo cuando llegan los turistas a ver el guggenheim en su alrededor igual hay otros comerciantes que creen que tienen una gran oportunidad

o en san sebastián igual hay algunos que creen que si

en julio y en agosto determinados días y determinadas fechas en fin de semana tienen que aprovechar esa afluencia turística para que los turistas gasten aquí

y hay que darles oportunidad para que gasten aquí y generen economía aquí

y los pequeños comerciantes necesitamos oportunidades no limitaciones y lo que hay que buscar es a través de la regulación primero

y a partir de ahí también poner encima de la mesa medidas para proteger a aquellos que lo están pasando mal pero como le digo tenemos muchas cosas que hacer aquí antes de pensar que el problema o la solución de los comercios del pequeño comercio hoy está en relación con la libertad de horarios ese es un debate absolutamente anticuado aquí lo que hay que hacer es saber exactamente

para que nuestro pequeño comercio sea cada día más competitivo para que se adecúe a las nuevas circunstancias y para que sepa aprovechar las nuevas oportunidades de negocio en este momento posibilitando yo creo que ese es el debate el debate sobre el pequeño comercio está ahí y desde luego discutir sobre las prioridades de este gobierno en función de qué hace con el dinero público y a quién está dispuesto de ayudar
con los recursos de todos nada más eskerrik asko oyarzabal jauna

agradecer al señor oyarzabal que haya centrado bastante el debate

liberales en lo económico y posiciones sociales me acusa de estar en los años ochenta

cuando el liberalismo era la ideología dominante y se pensaba que el estado a reducir al máximo luego se avanzó estado social protección social etcétera

madrildik ez quién ha puesto sobre la mesa la declaración de zonas de gran afluencia turística madrid

europa o sea el gobierno vasco madrid madrid europa europa qué va a decir que es el tratado

al final lo que no quieren es ustedes dar la cara delante del comercio delante del comercio y no me llame anticuado y diga que tengo un concepto anticuado del comercio

porque yo he estado muy recientemente y los que están ahora a día de hoy gestionando las asociaciones de comerciantes

están frontalmente en contra de cualquier liberalización de horarios por tanto no estoy hablando con un discurso anticuado y no estoy hablando con un discurso ajeno

usted no forma parte de la comisión de economía de esta cámara de la que forma parte yo por tanto no le puedo reprochar que no me escuchará

precisamente recriminaba al gobierno vasco la falta de interés y de inversión económica en el sector del comercio

únicamente de los presupuestos fui yo la única persona o el único grupo que recriminamos precisamente esa dejación porque se puede sacar dinero para el sector de comercio de muchos sitios

se puede sacar ahí ahí sí que hay miles de millónes para invertir en el sector del comercio y

la verdad es que es la única inversión que hace el estado en euskal herria

en infraestructuras de la historia y va a ser el mayor fiasco en términos económicos

de este último mes de septiembre son los últimos datos que existen no lo van a ver ustedes se lo voy a leer

la evolución de la población activa ocupada en el sector del comercio por comunidades

la primera comunidad que liberalizó el comercio paradigma de no hay ningún límite a la libertad claro eso es lo que dicen pero en la práctica es la ley de la selva para que los fuertes

se coman a los pequeños aquí hubo una frase bastante ocurrente

el problema que tenía es que le sobraba mes al final del sueldo

son horas de tiendas abiertas después de que se les haya acabado el dinero para consumir en las tiendas

donde iban a venir miles y miles de turistas a comprar de todo vinieron diez mil finlandeses a bilbao y no compraron un peine y los pocos que tenían expectativas

el turismo se adapta a los sitios a donde va y un modelo de turismo

positiva de ingresos y recursos para este país pero un turismo que no nos venga a cambiar ni nos venga a convertirnos en esclavos nosotros mismos y autoexplotarnos

muy fuertes para las personas que trabajan tanto por cuenta propia como por cuenta ajena

es que nadie del sector está de acuerdo en ello eta proposamen honekin

sí gracias vamos a ver los socialistas vascos pensamos que del ámbito del comercio

ya un par de años a golpe de reales decretos y de leyes que bajo títulos como medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad o

o el título de medidas para el crecimiento la competitividad y la eficiencia

en las potestades autonómicas que existen desplazándolas de modo absoluto y excesivo y que dejan en este caso al gobierno vasco como un simple ejecutor de la política que establece la administración central y por lo tanto se están desaprovechando y

se están desaprovechando las oportunidades que el propio autogobierno nos brinda en el caso de euskadi los socialistas sí creemos que hace falta

porque estamos convencidos que es posible conciliar en este ámbito posiciones de las instituciones de los municipios y también

en definitiva es posible yo no digo que sea fácil pero sí que es posible esa conciliación de intereses en una coyuntura económica como la actual cuando desarrollemos realmente

y el grupo socialista ante el proyecto de ley que presentaba el gobierno vasco y las alegaciones que se habían emitido por diversas entidades

inapropiada que era claramente mejorable antes de que llegase a este parlamento porque nosotros consideramos que la ley de cuarta modificación

debe plantear una regulación mucho más adaptada a los intereses de los municipios y también una regulación adaptada y coordinada con la necesaria modernización y el impulso de la competitividad del sector de la distribución comercial en euskadi y eso es posible

no hay otro modo señor casanova si antes de la discusión parlamentaria aquí con

los dos reales decretos el veinte barra dos mil doce de trece de julio y el real decreto ley ocho barra dos mil catorce de trece de julio

vasco para que la legislación autonómica reconduzca la situación y concilie esos intereses de las partes afectadas el proyecto de ley que veamos en este no va a ser el anteproyecto de ley de cuarta modificación que tenía el gobierno en mente

cuando se dice que va a necesitar del acuerdo plenario de los ayuntamientos que soliciten esa declaración de zona de afluencia turística y también va a necesitar digamos

más representativa a nivel local yo creo que son los dos elementos las dos piezas claves que pueden permitir el hecho de que haya ese consenso y esa conciliación por lo tanto

ajustes a problemas que se puedan plantear pero creo que la regulación será bueno porque va a generar

para todos iguales para todos los municipios de euskadi y eso es importante que los propios municipios sepan que tienen capacidad para desarrollar y para impulsar la economía de sus localidades y me parece que es consustancial lo que estamos tratando aquí

sobre las grandes superficies y el pequeño comercio yo creo que tenemos un pts desde hace muchísimo tiempo tenemos

desde hace ya mucho tiempo permítame un matiz toda la posibilidad que determinadas ciudades que cumplan las condiciones de ser

destino de cruceros patrimonio histórico etcétera etcétera eso está

eso está en el decreto estatal también está en el anteproyecto que ha preparado el gobierno vasco y que deberá de remitir a esta cámara como proyecto pero nosotros lo que hacemos es introducir a la hora de poner en práctica esa

de afluencia turística lo que hacemos es pretendemos introducir algunas garantías de cara al pequeño comercio y esas dos garantías son como ha comentado la señora corcuera que la declaración

de afluencia turística en un determinado municipio tiene que venir

con la petición del ayuntamiento por mayoría del pleno del ayuntamiento y también con la aceptación de la asociación

en cuestión o que esté relacionada con ese municipio interpretazio desberdinak ditugu casanova jauna eta orain

muchas gracias señora presidenta no pretendía abrir un debate en relación con las grandes superficies

pero es verdad y no se nos puede olvidar que

y de medianas superficies por supuesto que ha incidido ha tenido una incidencia decisiva en el panorama

y es verdad que eso ha condicionado y ha puesto en riesgo también la viabilidad de muchos

los centros de las ciudades los centros de las capitales se han visto resentidos comercialmente

ha habido muchos cierres en los centros de las ciudades nosotros hemos apostado siempre

de los cascos urbanos y de apoyo al pequeño comercio efectivamente en esas zonas que más han sufrido desertización comercial

superficies nosotros entendemos que efectivamente ahí hay que regular y hay que dar oportunidades a los pequeños comercios oiga que la regulación venga señor casanova

es que queremos que venga de la mano del acuerdo con los comerciantes pero tenemos que dar una oportunidad para que hablen los comerciantes afectados no otros no podemos hablar con quienes piensan que la solución es oiga este que tiene una oportunidad de salvar su negocio

obtener negocio de los turistas no a este

no vaya a ser que le vaya uno de nuestro pueblo a comprar por ahí no tenemos que ver exactamente qué parte en este momento del pequeño comercio lo está pasando mal y tiene una oportunidad y tenemos que negociar con ellos cuáles son

que les permita aprovechar esas oportunidades oportunidades para el pequeño comercio oportunidades también para los consumidores

los consumidores mayor libertad de horarios

también puede significar más puestos de trabajo lo que tenemos que tratar es de poner en marcha medidas que ayuden a modernizarse adecuarse

para ser más competitivos y más atractivos a los pequeños comerciantes y eso exige dinero recursos que el gobierno vasco

no que nos quedemos en debates estériles en relación con limitar

y poner puertas al campo en el siglo veintiuno las directivas europeas los ejemplos que tenemos

es que por ahí va el futuro por adecuarse por aprovechar oportunidades de verdad seguramente nos podremos encontrar en el debate de la ley pero creo que es necesario

que está bien planteado los decretos del gobierno de españa en relación con limitar a dos ciudades en euskadi bilbao y san sebastian

el pnv ha abierto el debate a todos los municipios tendremos la oportunidad de que cada uno nos podamos retratar sinceramente creo que hoy el futuro también del pequeño comercio pasa por más apoyo más recursos para su modernización pero desde luego también pasa por buscar un equilibrio entre libertad y protección no solo

mesedez tratare de hacer el trámite lo más rápidamente posible pero algunas cosas tengo que decir

dos semanas en las cuales hemos discutido un tema que se está discutiendo desde hace ya bastante tiempo pero

de la negociación y lo que se haga el mes que viene será para otros veinte años por lo tanto es necesario dados los indicios que hay que no son nada halagüeños

en la negociación con la fundación solomon el dar un impulso

para que la opinión de este parlamento que cristalizó unas resoluciones y recomendaciones de una ponencia parlamentaria ad hoc sean

por nuestras instituciones en esa negociación y digo que

en bilbao que el guggenheim es un éxito que el guggenheim es un éxito comercial que tiene buenas exposiciones y que atrae

del resto de españa y del resto del mundo entonces lo que planteamos es una negociación que reequilibre las situación

solomon es decir que las capacidades de actuación de las administraciones vascas sean

algunas porque ahora mismo no deciden nada lo que hacen las administraciones vascas ahora es pagar

se puede resumir el segundo aspecto principal de lo que se debería de conseguir en esta negociación en que el guggenheim bilbao adquiera

vasca no en mayor número porque siempre que décimos esto dicen es que hay no sé cuantas número de piezas de obra

pero es que cualquiera de las obras extranjeras que hay valen para comprar

más la obra vasca que hay estamos hablando de algo que sea significativo no tiene que ir al museo pero que haya más oteiza

de envergadura internacional en el guggenheim y que se vea es decir que afuera en vez de poner siempre también

que llame la atención en cualquier caso digo que los indicios no son buenos y por eso estamos hoy aquí porque la consejera en la respuesta a mi interpelación de esto que estoy planteando no dijo nada tenía la oportunidad no de decir lo que va a hacer finalmente en la negociación pero al menos igual que apuntó

podía haber aportado alguna en este sentido se hubiera quedado todo tranquilo

y el hecho de que no lo haya dicho indica que eso o no lo está intentado

o ya veremos el señor bidarte también a finales de octubre dijo públicamente en una charla que

dentro del espíritu y deseo de mantener la relación y este creo

que están haciendo nuestras instituciones con la fundación solomon esto

entregando la cartera de entrada va mal porque están diciendo que todo lo que hagamos y que además no tiene buena pinta es por el deseo de mantener la relación y el otro también tiene deseo de mantenerla no se equivoquen porque no estamos como hace veinticinco años que parecía que la marca guggenheim podía ser un banderín de enganche para

no no es que en estos veinticinco años y ahora hablaré de finlandia el guggenheim no ha logrado en poner en pista otro proyecto pero sí tiene cinco fracasos

cuando salga estamos hablando de que ahora mismo aporta bilbao a la marca guggenheim

luego eso debe ser una simbiosis y debe de recomponerse a la situación de forma que responda

aparte de que la señora uriarte no dice nada y que el señor bidarte dice que

y será para sobre todo en relación a mantener la relación en finlandia están negociando un nuevo museo en

ha publicado un reportaje sobre la negociación de finlandia

y ponemos bilbao podía ser exactamente el debate

que estamos teniendo aquí exactamente en finlandia están cuestionando que para la marca tienen que pagar

lo mismo están cuestionando que cueste ciento treinta millónes de dólares el poner en marcha el guggenheim construcción todo esto

finlandesas están cuestionando que en el contrato que se está pergeñando

es decir es la discusión de bilbao en finlandia esto es un mal indicio porque está teniendo lugar ahora

respuesta y como buen negociante que es que no sé si los que tienen en frente lo son

si no hay dinero público esto no pita porque no se fía de que el dinero privado

el asunto y la marca hay que pagarla pero bueno que hagan ustedes una fundación privada y con dinero privado la marca pero claro va a cobrar la marca es decir tiene unas posiciones

o da alguna solución que puede permitir a los otros pagar de otra manera pero él sigue en sus trece es decir hay que negociar entonces desde el principio con ideas claras y voluntad de exigir al otro también una contraprestación y por lo que estamos viendo y por todos esos indicios esto no va a ser así

en este parlamento de ese asunto otra vez que nadie diga después de la votación de hoy que efectivamente el gobierno vasco hizo suyas las resoluciones de la ponencia las llevó a la negociación y fue imposible ya mantener la relación

estamos advirtiendo con tiempo hay posibilidades y estamos dando el último aldabonazo político para impulsar una solución que sea la mejor

para el futuro son veinte años más vamos a ver cómo queda para terminar solo citar algunos de los aspectos más concretos de lo que he dicho antes que son

para tener en cuenta en este asunto fíjense la fundación solomon dirige el museo en su conjunto y en su conjunto quiere decir exactamente

que la fundación administrará y dirigirá el museo y lo hace

no quiere decir que directamente gestione todo que gestiona mucho sino que nombra al director también dirige la gestión de las colecciones y la programación artística no solo la acción del museo de las colecciones y la programación artística hasta tal punto lo hace que lo hace desde nueva york

no hay propuestas artísticas para ordenar el discurso museístico del museo guggenheim de bilbao porque lo hace la fundación solomon de nueva

la pagan las instituciones vascas todos los años aportan dinero para ello importantes siete millónes de euros pero la tenedora en la que están las dos instituciones vascas

cuando nueva york hace la propuesta de compra es decir

es nueva york quien dice lo que hay que comprar entonces sí la tenedora las administraciones vascas pagan los puestos directivos como el del director serán contratados por el museo la recomendación y con la aprobación previa por escrito de la fundación solomon en fin

en su relaciones cuando se expande por el mundo pero es verdad que

la situación de guggeheim bilbao su éxito su aportación a la marca

solomon todo ello indica que nuestra posición negociadora es fuerte si sabemos y queremos negociar

únicamente decir que estoy de acuerdo con la moción planteada por el señor reyes y creo que como una mayoría de grupos o por la totalidad de los grupos votaré

sí gracias señora presidenta también con brevedad el planteamiento positivo en relación con la moción que presentaba el señor reyes yo no voy a repetir argumentos nosotros trabajamos en este parlamento en la legislatura pasada

pero en junio de dos mil doce trabajamos a fondo y lo hicimos constructivamente

se asumió por parte del gobierno y por parte de los grupos parlamentarios que había que tener en cuenta las consideraciones y recomendaciones de la ponencia y que el gobierno así actuaría

lo aprobado en el parlamento vasco fue muy claro en relación con asumir esas cuestiones y

las recomendaciones del dictamen de la ponencia para el análisis de la trayectoria del museo guggenheim e insta al gobierno vasco a que las incorpore como propias en el proceso de conformación de la posición vasca

para el acuerdo de gestión que deberán firmar en diciembre de dos mil catorce estamos en diciembre de dos mil catorce

dentro de muy poquito es el momento de hacer o de no hacer el pronunciamiento de junio de dos mil trece fue muy claro y también el parlamento

fue ese trabajo parlamentario de ponencia que partiendo del conocimiento del análisis y el reconocimiento del éxito quiso que la parte vasca

veinte años en la realidad guggenheim yo le decía el otro día cuando también preguntaba a la consejera en el pleno de control que antes tuvo la interpelación

el otro día que lo que buscábamos de alguna manera con las consideraciones y con las conclusiones y con las recomendaciones

es pasar de ese tratamiento de tú a usted en el que nos hemos instalado durante estos últimos años en relación con la parte vasca era el tú la parte americana era el usted pasar de tú a tú o

eso era lo que teníamos que conseguir después de ese trabajo en ponencia después de habernos adelantado después de haber hecho un buen trabajo y de que el parlamento lo reconociese este es el momento

de seguir instando al gobierno a que se ratifique en esas

y que actúe en ese sentido las consideraciones y las recomendaciones ahí están hemos hablado

no es necesario volver a repetir yo el otro día también hacía

una valoración y es por qué nos tenemos que interesar tanto desde este parlamento en relación con esta cuestión pues yo les digo por qué este convenio se va a firmar para veinte años más este año tenemos presupuestados en el parlamento vasco tres millónes ochocientos mil euros

eso a la misma cantidad que pueda dar la diputación foral de bizkaia y ustedes reconocerán

de mejorar la gestión del dinero público de esos ciento cincuenta y dos millónes de euros para veinte años es en lo que estamos trabajando por eso exigimos al gobierno vasco que acepte que asuma esas recomendaciones esas consideraciones que imponga

lo que la demostración de estos años de gestión conjunta y que
usted a usted o de tú a tú muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza